harrigarria iruditzen bazaigu ere déjenme a los pocos que están presentes

un poco en el tiempo y en el espacio vayamos al veinticinco de enero del dos mil once también conocido como el día de la ira

miles de manifestantes llenan la plaza tahrir en el cairo

protestan porque están hartos protestan por la corrupción protestan por los salarios de miseria

algunas cosas cambian los sucesivos gobiernos que siguieron la caída de mubarak intentaron tomar medidas para calmar el malestar no entraré en detalles la historia es conocida y el resultado es más agrio que dulce

que sí quiero subrayar con el tiempo se consideró que uno de los escasos logros de aquellas protestas fue el aumento del salario mínimo

era mucho pues no pasaba de ser cuarenta y uno euros el salario mínimo a ser setenta y dos euros ya ven podría parecer poco pero

veolia aquello le pareció un atropello una salvajada veolia gestionaba por aquel entonces las aguas residuales de alejandría un servicio privatizado por supuesto y pagaba el salario mínimo a la mayoría de sus empleados cuarenta y uno euros

de subir el salario mínimo y tener que emplear a sus empleados y sus empleadas la cantidad de setenta y dos euros de nuevo salario le pareció inasumible por lo que el veinticinco de junio del dos mil doce denunció

la denuncia de veolia fue presentada en nombre del tratado de inversiones firmado entre francia y egipto

fue que la nueva ley laboral contravenía los compromisos adquiridos en el marco de la cooperación público privada firmada con la ciudad de alejandría para el tratamiento del agua en otras palabras el aumento del salario mínimo se consideró un freno

es así tal cual y aún persiste el litigio

tal vez se pregunte por qué hace veolia semejante cosa pues es muy simple lo hace porque puede

un entramado fuerte una arquitectura jurídica internacional de ámbito privado que algunos han bautizado como lex mercatoria que protege a las grandes empresas que son las únicas que pueden afrontar estos procesos judiciales

nuestros puntos de vista están alejados y así lo hemos demostrado cuando han llegado las votaciones en bruselas euskal herria bildu votó no a la confirmación del tratado así como los partidos que están en elkarrekin mientras que el partido popular y el partido nacionalista vasco

atención especial merece una vez más el partido socialista que una vez más voto a favor y sin unanimidad

en esta huida hacia adelante en la que se han metido elena valenciano

es un mal acuerdo pero que habían votado sí porque están a favor del libre comercio en cualquier caso

no ha sido la primera ni será la última batalla en este enredo de tratados en el que ustedes alineados con las necesidades del poder corporativo nos van a colar

y digo colar porque me temo que hoy se va a demostrar una vez más que susan george tenía razón cuando llamaba tratados vampiro a estos tratados

estos tratados necesitan de nocturnidad para actuar de desconocimiento del público se esconden de los focos y como los vampiros si los sometes a la luz quedan desactivados y mueren

por eso no puedo ocultar mi sorpresa incluso mi indignación por la postura que ustedes han anticipado que van a defender en la transacción

algo muy básico diría que hasta elemental se pide concretamente constituir una ponencia en relación con los acuerdos de libre comercio que están siendo últimamente negociados y en su caso aprobados entre la unión europea y diferentes estados o áreas económicas

u otros al objeto de plantear las propuestas y opiniones de los distintos colectivos y agentes

de garantizar el conocimiento público de dichos acuerdos y para que este parlamento esté informado antes de emitir consideraciones pronunciamientos o peticiones

entonces escuchar a agentes a personas expertas que haya un conocimiento público y que este parlamento esté informado antes de pronunciarse o pedir algo al respecto a esto es a lo que ustedes van a decir no y esto solo puede tener un motivo ustedes lo que tienen es pánico al debate público ustedes cuando dicen trasparencia buscan nocturnidad ustedes intuyen

y se lanzan sin miramientos porque sus intereses de partido son indistinguibles del beneficio empresarial y se limitan a ir diciendo una cosa o la contraria según venga el debate que les presentemos siempre que no se perjudique

seguramente la unión europea ha aprendido muchas lecciones acerca de la transparencia y la responsabilidad durante todos estos procesos de negociación y las críticas que han sido objeto

han hecho una aportación positiva en el sentido de avanzar hacia una mayor transparencia y control de la ciudadanía

y a la vez impedir aquí que se estudien sus desafíos en el parlamento

también queda lejos aquellas palabras de arantxa tapia la legislatura pasada

y decía aquello de que tenemos que considerar que las negociaciones sobre este tratado incluyen ámbitos que recaen además

y que las administraciones competentes y los parlamentos correspondientes deberán hablar o cuando decía además el gobierno vasco en ejercicio de la transparencia que reclama va impulsar la celebración de sesiones informativas con todos y cada uno de los agentes de la sociedad civil de este país

y dónde queda la voluntad y dónde queda esa transparencia aludida en el baúl de los recuerdos cuántas iniciativas de debate han presentado ustedes

dónde están las sesiones informativas o era todo una gran mentira hemen arazo bat baino gehiago ageri dira

eskerrik asko arratsalde on hoy debatimos sobre un tratado comercial en este caso con canadá intentamos poner con esta iniciativa con la moción de euskal herria bildu y con las

y taquígrafos se trata de debatir algo que para nuestra coalición debe ser fundamental porque va a incidir en la vida de todos y de todas

debatimos sobre si este parlamento puede debatir o no puede debatir sobre este

sosegado contando con opiniones o tenemos que pasar absolutamente del tema como parlamento

vasca esta propuesta trata de conocer opiniones trata de conocer informes trata de conocer propuestas y como decía mikel otero pensamos que el miedo que hay es ese miedo a esa definición que decía también

de que estos tratados eran como los vampiros que solo se le tiene que dar la luz

hoy parece lamentable que lleguemos a esta situación y que se vaya a rechazar una propuesta tan sencilla y tan simple como la que queríamos presentar

la participación sobre un debate que puede afectar a sus vidas porque sí que voy a aprovechar el tiempo para determinar algunos de los aspectos que nos preocupan

de este acuerdo en su intervención el consejero azpiazu el pasado tres de febrero

de derechos de aduanas especialmente productos industriales en apertura del mercado de servicios con las garantías de no discriminación de inversores llegó a afirmar el ceta no afectará a nuestro acervo pues bien aquí venimos a negar la mayor porque estos tratados de nueva generación lo que pretenden es lograr eliminar las barreras arancelarias

mínimas en la economía mundial salvo casos muy concretos lo que pretenden eliminar es una cosa que los neoliberales llaman obstáculos al comercio como pueden ser

control de precios restricciones en las cuotas a la política

fitosanitarias o normativa laboral eso es lo que buscan reducir estos tratados y no otros arancelarias que prácticamente ya ni existen

que es donde encontramos la literatura que esconde el tratado que se habla cómo no tenía que aparecer del único objetivo que es la maximización de los beneficios ahí está

en el día de hoy porque se viene diciendo como una matraca que la cooperación reguladora que

dice que las partes entrarán en los procesos de cooperación reguladora que toda la vida han sido tribunales de arbitraje que

voluntaria pero si seguimos leyendo el tratado hay otros instrumentos que sí establecen ese carácter obligatorio dónde está por tanto

como se puede comprobar esos tribunales sí que van a existir

y una de ellas es su condición de tratado vivo y esto qué quiere decir que a través de los comités

vías para el desarrollo de su contenido de manera posterior a su aprobación es decir que el congreso de los diputados en el mes de junio va a aprobar el tratado

sabiendo que después se va a modificar hurtando de nuevo el debate a la ciudadanía sin saber hacia dónde va a ir como se puede ver no solo ustedes pretenden dar este beneplácito bueno ni siquiera este beneplácito porque el debate ni se va a dar en este parlamento de que algunos en el gobierno tanto bombo le dan al concepto

sobre este tipo de cosas como otros parlamentos como el de valonia han hecho van a dar beneplácito a un tratado que puede mutar a no sabemos el qué que además se compromete entre otras cosas con un tratado

las normas del juego a mitad de partido seguramente el poder de las trasnacionales no afecta en nada a lo que vaya a cambiar

porque en euskadi también podemos sufrir alguna de sus consecuencias porque tampoco en esto evidentemente tampoco somos una isla

por unanimidad y otras por mayoría medidas por ejemplo contra el fracking pues bueno

hasta ahí bien pero en el capítulo cinco punto nueve hay una cláusula que supedita a esta a costes y eficacia qué va a valer más qué reclamaciones están haciendo a la mayoría de los tribunales de libre comercio sobre

contra la protección ambiental son las mayores denuncias que se están haciendo qué pesará más

en este tema que el setenta y cinco por ciento de las empresas mineras del mundo están registradas en canadá que no lo digo por decir que hay una riqueza muy importante en el país pero que también hay

flexibilidades fiscales que tiene porque también canadá tiene un derecho de libre acceso a las tierras de propiedad pública lo que significa que en canadá

comerciar con toda la tierra son muchas las organizaciones internacionales que han denunciado los abusos de estas compañías mineras y la indefensión ante la ley de quienes quieren investigar civilmente por ejemplo delitos cometidos pues bien este tratado lo que hace

que da facilidades para que eso se pueda dar también por aquí porque nos preocupa

del poder regulador del estado que ese poder regulador se minore entonces también podríamos preguntarnos sobre este tratado en qué puede beneficiar la firma a las personas que habitamos en euskadi en qué beneficia en nuestro sector primerio baserritarras ganaderos un acuerdo con canadá uno de los líderes mundiales en exportación de carne de vacuno cuando por ejemplo la unión europea ya ha accedido a que canadá exporte cincuenta mil toneladas adicionales libres de aranceles que decía antes que uno de los sectores que

en qué va a beneficiar eso a los baserritarras vascos y vascas porque el ceta también puede afectar a muchísimas cosas más

después pero no incluye salvaguarda por ejemplo de la protección a las pymes que también van a ser afectadas por este tratado columna vertebral de la economía

la protección laboral o por ejemplo las denominaciones de origen y da más facilidades más todavía de las que hay a la privatización de los servicios

que el del acuerdo de presupuestos del estado también hay una cláusula para impedir la remunicipalización pero ahora además de eso este tratado lo que hace es facilitar la privatización de los servicios públicos porque lo cierto como decía que esa cláusula social

de trabajo la reducción de los derechos de los propios trabajadores y trabajadoras porque se va a decir y estoy seguro aquí por parte de los tres partidos que van a votar en contra de esta iniciativa probablemente

el mundo que crea empleo que mejora las condiciones incluso laborales pero todos los datos indican justamente todo

pues bien estos y otros aspectos son los que queríamos debatir en una ponencia en una sencilla ponencia

gente que llamáramos nosotros y gente que llamaran ustedes a hablar

porque creemos que tienen que ser debatidos y aclarados porque estoy seguro que en esta intervención

ese tratado una ponencia donde se pudiese aclarar y debatir todos estos puntos oscuros

tratados si no tienen miedo si no tienen miedo a este monstruo que se destruya voten a favor si no tienen miedo a que la ciudadanía conozca lo que firman en europa con la nariz tapada como ha dicho el señor

en su conjunto votó a favor del tratado sí el español si no tienen miedo a este tipo de circunstancias abramos una ponencia debatamos opinemos y

este tratado de libre comercio solo queremos abrir el debate pero ni siquiera esa ventana de oportunidad se puede abrir en este parlamento eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

muchas gracias señora presidenta el acuerdo económico y comercial global ceta

las que utilizan es un acuerdo comercial entre la unión europea y canadá desde mil novecientos setenta y seis la unión europea tiene acuerdos comerciales con canadá en el noventa y siete acuerdo de cooperación aduanero

en el dos mil tres acuerdo de vinos en el dos mil siete se acuerda realizar un estudio de mayor liberación en el dos mil once se hace el estudio de impacto

y en canadá y en el dos mil diecisiete el parlamento europeo

y hoy como en el primer punto de esta mañana estamos discutiendo algo que es falso

vasco llegara a un acuerdo con el gobierno de españa en el cupo ustedes metieron hace varios meses esta moción para que antes de que el parlamento

pero es que en febrero ya lo aprobó el parlamento europeo vamos a abrir aquí una comisión para debatir oiga lo hemos debatido todos

sabemos que están en contra sabemos que están en contra

no vamos a hacer una ponencia que vengan expertos oiga nos pasamos cuatro años en la legislatura pasada con el ttip como era con yanquilandia estaban todos en contra

que en dos años estaba colgado en internet en la página de la unión europea el acuerdo con canadá pero claro de repente llegan a la contradicción hay va nos oponemos a este y se acaba de aprobar el de canadá

cuando yo era más joven la izquierda era internacionalista era la izquierda

la mano derecha más arriba y otros con la mano izquierda más arriba

era internacionalista y ahora resulta

coinciden con la extrema derecha más nacionalista del mundo mundial y nos hacen los mismos planteamientos

tenemos con colombia con perú con corea del sur con montenegro y serbia estos son los últimos con albania y bosnia desde el dos mil ocho con marruecos sudáfrica israel y méxico andorra san marino turquía palestina islas feroe y túnez y los primeros de la unión europea

porque era la zona más europea jamás

pronunciarse en contra de ninguno de esos tratados hasta que la súper izquierda que tenemos en este parlamento representada en dos grupos ha decidido que esto es muy malo pues yo les tengo que decir que entre otras cosas en los negocios

la unión europea importó veintiocho mil millónes de euros en el dos mil quince y exportó a canadá

millónes de euros se supone que este acuerdo va a incrementar en un veinte por ciento eso

y a las medianas empresas las multinacionales no necesitan acuerdos ya están en los sitios pero parece que hay que recordárselo a ustedes continuamente

disminución de aranceles reducción de costes a empresas permitir que empresas europeas entren en el comercio de los servicios con excepción de qué servicios porque está en el tratado es que

sanitarios educación servicios sociales distribución de agua y servicios audiovisuales para oponerse a algo no hace falta mentir

digan algo razonable para oponerse pero no mientan

para más de ciento cuarenta indicaciones geográficas europeas de productos alimentarios o vinícolas nuevo sistema de tribunal de inversiones que garantice que no le vayan a robar a nadie las inversiones porque de repente aparece inmaduro

y roba al personal y no queda al albur de las multinacionales como usted dice

la unión europea la que va a nombrar los jueces y eso viene en el tratado

todos sabemos leer de verdad necesitan mentir tanto para oponerse algo para hacer demagogia barata porque de repente se han vuelto nacionalistas

está en el tratado está escrito

dos años publicado en la página nadie ha dicho nada y vienen ahora porque les da vergüenza como si

no se nos ha colado nadie y este es un debate

de demagogia barata nos dicen hoy no venimos a pronunciarnos

lo hemos votado ustedes han votado en el parlamento europeo ustedes han votado en el parlamento europeo

necesitamos que vengan expertos oiga hasta varoufakis nos trajeron la legislatura pasada aquí para decirnos cómo no había que pagar la deuda

un poco de rigor y de seriedad aquí no hay no necesitamos más expertos y han desfilado en este parlamento han desfilado y en el parlamento europeo y hemos votado

y ahora qué falta pues como ha dicho el representante de podemos que el congreso de los diputados lo ratifique punto

pero nos traen aquí el debate este que es falso ya lo hemos tenido en el parlamento europeo

para decir que ustedes son muy qué que claro dice

dos años llevamos diez años de negociación con canadá dos años colgado en la página web de la unión europea

y se les pasó como era lo de estados unidos el maligno verdad nos dice que nos da miedo debatir pero cómo nos va a dar miedo debatir que estamos a favor

vamos a votarle en contra aquí que vamos a votar a favor en el congreso de los diputados oiga cómo que nos da miedo no tengo ningún problema estamos a favor

que también se oponen ustedes sí sí estamos a favor

porque este es el acuerdo de la unión europea con el primer país económicamente importante porque está dentro de los diez más importante del mundo económicamente aunque solo sean treinta y cinco millónes de habitantes

de que los países menos desarrollados puedan vender sus productos en europa y que se desarrollen sí somos partidarios ya sé que ustedes no

siempre da lugar a lo mismo ahora resulta que canadá es el ogro del mundo

fuera de la unión europea dices haber qué país con qué país de fuera de europa culturalmente socialmente pues los europeos nos podemos sentir más identificados

es complicado porque incluso países de sudamérica tienen un concepto muy diferente del que tenemos aquí

un país filibustero en el que el medio ambiente no se cuida

china lo ha cuidado venezuela es un lujo

y los canadienses van a venir a pervertir la unión europea

de verdad están intentando vender esto ustedes pues mire

y me ha dicho que los baserritarras le diré que desde hace muchos años lo sabe pero yo sí los baserritarras vascos llevan comprando semen de frisón canadiense

vascas y gastándose una pasta que a lo mejor ahora

sí gracias presidenta vamos a ver la moción que hoy nos plantea bildu

y la iniciativa que han transado bildu y podemos viene a decir que

esa ponencia extensiva a los acuerdos últimamente negociados y en su caso aprobados y para los socialistas vascos esto es una ocurrencia más señor otero

esta ponencia ni este asunto cuando han pasado siete meses desde que se firmó ese acuerdo han pasado tres meses desde su aprobación por el parlamento europeo y tres meses desde que bildu registró su moción el siete de febrero en esta cámara para su tratamiento en el pleno de hoy

necesidad de la inmediatez y de la urgencia en esta ponencia

está en las cortes generales en concreto en la comisión de asuntos exteriores para dictaminar

por lo tanto nosotros entendemos que ha habido momentos y tiempos para que estos temas se trataran

en el último segundo este acuerdo de libre comercio con canadá ha sido apoyado por los socialistas españoles porque frente al proteccionismo de trump y al proteccionismo de le pen apostamos por una globalización regulada y progresista para preservar nuestra posición en el mundo

con estándares similares y en ocasiones superiores a los de europa en su defensa del estado del bienestar la sostenibilidad

no creemos que se trate aquí de un asunto de problemas de soberanía ni de compartir soberanías como decía antes podemos ni se trata de un problema de que peligran los derechos humanos para nada el acuerdo preserva inequívocamente los estándares de la unión europea en protección social

y de derechos de los consumidores se reconoce explícitamente el derecho a no rebajar los estándares laborales ni la protección medioambiental para promover el comercio y la inversión la historia ha demostrado que las economías abiertas crecen más rápidamente y disfrutan de mayor riqueza y prosperidad y en este caso estamos discutiendo

la economía vasca pero también la economía española y la economía europea y este acuerdo beneficia también a las pequeñas y medianas empresas que son las que tienen mayores dificultades en salir al exterior en poder comerciar con sus productos superando las barreras europeas

por su lugar de origen y de calidad de las cuales veintisiete son españolas por primera vez las empresas europeas podrán acceder a los mercados de contratación pública canadiense

sin duda alguna ha sido mejorado y también por la aportación de los socialistas europeos y por eso hemos conseguido avanzar notablemente en transparencia durante el proceso de negociación se ha mejorado el contenido y el acceso a los documentos y se ha exigido a la comisión información regular de ese proceso de todo el proceso en el parlamento los documentos sobre el acuerdo se han publicado en internet y el trabajo

constante y continuo los socialistas españoles también hemos logrado que quede perfectamente recogido en el acuerdo la exclusión de los servicios públicos como el agua la sanidad

el pleno derecho de los gobiernos a prestar los servicios que consideren

la no exigencia de privatizar ningún servicio el derecho de los estados para devolver al ámbito público servicios que estén privatizados también consideramos de gran importancia haber conseguido que se incluya un ambicioso capítulo de desarrollo sostenible que incorpora los mayores niveles de protección laboral y medioambiental y también normas sobre responsabilidad social corporativa de las empresas canadá se ha comprometido a firmar las principales convenciones de la oit

y se ha iniciado el procedimiento de ratificación del último convenio sobre el derecho de sindicación

la declaración interpretativa conjunta establece que ni la unión europea ni canadá podrán rebajar sus leyes laborales con el fin de promover el comercio o atraer la inversión

no altera los derechos de los trabajadores a negociar a celebrar y a aplicar convenios colectivos

en asuntos laborales relacionados con el comercio que sean de interés común incluso mediante la participación de la oit y el diálogo sostenido

fomenta el comercio de una manera que beneficia a los trabajadores y apoya las medidas de protección al trabajo se ha conseguido finiquitar

implantándose un sistema de tribunales de inversiones público similar al tribunal de justicia de la unión europea con carácter permanente con jueces públicos con jueces independientes y sujetos a un estricto de incompatibilidades y con un código de conducta para la resolución de conflictos entre inversores y estados y a modo de resumen para los socialistas vascos al igual que para los socialistas españoles ceta es un acuerdo

que tiene en cuenta las preocupaciones de la unión europea que demuestra el compromiso de la unión europea y canadá para trabajar juntos y diseñar una agenda comercial basada

en su forma actual de acuerdo mixto conlleva además una declaración interpretativa conjunta de carácter vinculante para clarificar la protección de las inversiones

el blindaje de los servicios públicos la protección de los derechos laborales sociales y medioambientales por lo que reúne las condiciones para ser respaldado por los socialistas y en lo que respecta a euskadi el ceta representa una mayor integración entre dos economías de la que cabe esperar ganancias económicas con garantías de aplicación de los estándares europeos de seguridad y de calidad lo decía el consejero de hacienda en el momento de su interpelación

va a ser limitado porque en dos mil catorce solo el cero coma cinco por ciento

tuvieron como destino canadá eso supuso ciento cinco millónes de euros y resultaba ser el trigésimo sexto país en el ranking de destinos para la exportación vasca y en el capítulo de las importaciones estábamos en noventa y nueve millónes de euros

y el trigésimo primer país en cuanto a la posición que ocupábamos pero por esa misma limitación también es una oportunidad para euskadi

y los socialistas vascos no vamos a apoyar la moción de bildu ni la enmienda que han transado con podemos porque primero como les he comentado no se ha motivado para nada al menos con rigurosidad

en un cajón durante tres meses y no haberla presentado ni antes del acuerdo firmado en octubre de dos mil dieciséis

por el pleno del parlamento europeo no la apoyamos porque

efectivamente se puede y se debe hablar de todo pero sinceramente señor otero los que estuvimos aquí como parlamentarios en mi caso como parlamentaria la pasada legislatura al hilo del ttip no vimos la necesidad de creación de ninguna ponencia para debatir

tampoco la creación de una ponencia para su negociación y ni siquiera bildu entendió que era necesario generar ninguna ponencia

ese planteamiento en esta cámara ni sobre el ttip

ni sobre el ceta ni siquiera nos trajo a expertos

y cree usted que no debatimos sobre los acuerdos de libre comercio en general

que efectivamente lo hicimos debatimos y mucho estuvimos en muchas comparecencias

habla en pleno y en comisión tratamos

en pleno y en comisión y en diversas ocasiones ya se encargó como le digo bildu

y esos agentes sociales para darnos a conocer en aquel momento

y la conclusión de una ponencia no garantiza el conocimiento público de los asuntos

en multitud de ayuntamientos de euskadi el tema está más que socializado y lo saben ustedes

en muchísimos ayuntamientos y también en las tres juntas generales de los tres territorios históricos

hacernos partícipes a todos los grupos de una trampa todos los aquí presentes tenemos ya

porque lo hemos manifestado en el parlamento europeo porque además lo vamos a manifestar en las cortes generales y las negociaciones del ttip y del tisa sabemos que están fuera de juego

felicitó en su elección y mostró su absoluta disposición a seguir cooperando para estrechar relaciones recordando

comerciales existentes entre los dos países se refería a estados unidos y al país vasco no le digo más pues igual en lugar de proponer una ponencia en el parlamento

algún grupo de trabajo interno para determinar cómo es posible que bildu y podemos abracen las tesis proteccionistas de trump y de le pen cuando sus discursos no se alejan
cuando sus discursos berbotsa isiltasuna mesedez claro es que yo soy respetuosa ustedes no

ustedes no bueno pues como les digo para determinar cómo es posible

cuando sus discursos no se alejan tanto de los de ellos e incluso utilizan argumentos similares y respecto para que quede bien clarito respecto a lo comentado por el señor otero con relación a elena valenciano elena valenciano dijo

este acuerdo no es el mejor posible no es el mejor posible
corcuera anderea amaitu mesedez termino es una frase

pero estamos en la dirección adecuada así que seamos rigurosos

ez eta bueno por cierto su intervención y argumento es una copia

de los argumentos del señor matute cambiando el acrónimo ttip por el acrónimo de

y como usted mismo lo ha dicho en los últimos treinta años de la unión europea ha firmado más de mil trescientos tratados de libre comercio

yo a esta cámara hace poco en el debate sobre colombia

no están hechos para favorecer a tal o cual transnacional o multinacional están hechos

al consumidor para favorecer a la libre competencia y para impedir el proteccionismo como el del señor donald trump el ceta se ha negociado para evitar monopolios monopolios que pueden

los contratos públicos y dejar la puerta abierta a cantidad de

entrar en mercados a los que hoy por hoy no tenían acceso

cuando la comisión europea inició el proceso en el año dos mil nueve

en la sostenibilidad animó a todas las partes interesadas a presentar observaciones sobre todas las cuestiones que afectasen a la sociedad civil y a los distintos sectores económicos y sociales de la unión europea durante los cinco años de negociaciones la comisión ha mantenido multitud de reuniones y diálogos con la sociedad civil que usted y yo no estuviéramos invitados a dicha reunión no quiere decir que fuera secreta eta gero beste alde batetik paralelamente

de otra forma sino ha colaborado de forma muy estrecha con el parlamento europeo informándole sistemáticamente de todos los avances de las negociaciones

en febrero del dos mil catorce se cierra la negociación

y del parlamento pero también de la corte suprema de alemania

y no han encontrado absolutamente nada que fuera en contra del derecho europeo nada en contra de nuestro modelo socioeconómico se firmó el treinta de octubre del dos mil dieciséis por parte de los veintiocho estados miembros bélgica y valonia incluida

un anexo en la parte que afecta únicamente a bélgica firmaron todos los estados miembros los del norte del sur del este del oeste conservadores progresistas

todo el mundo firmó el acuerdo por unanimidad y como se ha dicho aquí también el acuerdo permitirá eliminar el noventa y nueve por ciento de los aranceles dar

y adicionalmente quiero resaltar que el acuerdo respeta plenamente las normas europeas en materia como la seguridad alimentaria derechos del trabajador incluye todas las garantías necesarias para que el beneficio económico no vaya en contra de la democracia sino que vaya a favor del medio ambiente de la salud y de la seguridad de los consumidores es posible que haya algún tema

que puede afectar a un sector de forma negativa puede ser pero en su conjunto

es un tratado muy positivo para europa y por lo tanto muy positivo para euskadi y también lo ha dicho la señora corcuera el ceta está acompañado por un instrumento interpretativo aceptado por canadá que tiene el mismo

y que dice todo lo que no se permite como por ejemplo la prohibición de rebajar las normas sociales y medioambientales y el ceta afirma claramente que la definición de los servicios públicos pertenece a los estados

de privatizar pero también de nacionalizar un servicio en particular

protección de las inversiones derechos de propiedad intelectual etcétera no voy a repetir y también ustedes han mencionado el icbs el icbs desaparece desaparece y es remplazado por tribunales de inversión el ifs sí y esto

no se basará en tribunales temporales y tendrá jueces profesionales independientes

ustedes nos dirán cuándo les viene bien que les traigamos los temas

cuando no traemos los temas porque no los traemos y nos hemos despistado cuando los traemos porque a ustedes no les viene bien pero bueno el caso es que aquí van a votar ustedes un no redondo a que se cree una ponencia que trasciende

los que se han firmado y se pueden firmar

el documento interpretativo porque sino luego esto se me va a olvidar

de todo tratado debe realizarse en primer lugar atendiendo a su texto original y en segundo lugar a declaraciones y textos interpretativos con lo cual no está diciendo las cosas correctamente señor aguirre cuando dice que va a tener el mismo valor jurídico

cuando el informe de impacto que se ha aludido aquí no existe en castellano

y ese texto tan famoso del que hablan que está aprobado desde el dos mil catorce no ha estado traducido hasta hace seis meses

que esto viene de lejos y que está ventilado por ir por partes de las cosas que se han dicho

a trump no se equivoquen con trump y el libre comercio a lo que está diciendo la nueva administración americana y por favor déjense ya de demagogia barata y vinculaciones

porque benefician por igual a las grandes empresas de diferentes países y para el trump el tpp o el

son tratados multilaterales con muchos estados se considera a europa como muchos estados entonces lo que quiere es

o sea asimetría al máximo nivel así que por favor no

esa posición con la posición de euskal herria bildu porque no tiene nada que ver

si me da un poco de tiempo por partes señor damborenea bueno claro usted se ha venido muy arriba le veo lo da por hecho todo y usted nos dice a ver si yo le pregunto a ver si usted sabe leer y usted evidentemente contesta que sí y yo no sé hasta dónde sabe leer

porque usted sabe que hay veintisiete ratificaciones pendientes en europa para que entre en vigor con lo cual el debate sigue siendo completamente pertinente y una ponencia

perfectamente pertinente independientemente de

está claro y en mi pueblo también se cantaba por supuesto que sí se cantaba el internacional y se canta pero también en mi pueblo

el cara al sol entre otras cosas y últimamente hemos visto muchos cánticos me sorprende que el partido socialista no les haya llamado al orden por esas mofas acerca de la internacional y me va a dar poco tiempo pero yo sí que quería hacer

al partido socialista y ya que hoy iba de pancartas porque la señora rojo

de sus pancartas porque es muy bonito esta misma semana

y la misma señora mendia en su alocución decía y lo habría así decía una vez más nos sumamos desde el partido socialista

porque creo que defendemos las mismas cosas creo que defendemos las mismas cosas

dice que no asegura los servicios públicos que no asegura el empleo que es problemático con el mecanismo de disputas de inversor estado

que no establece un mecanismo de sanciones legales que castiga las infracciones de la legislación laboral y medioambiental

no se requieren derechos especiales para los inversores privados por lo que no es necesario establecer un tribunal de inversión especial pues a mí no me queda nada claro que ustedes defiendan lo mismo

es que ustedes en este tipo de casos siempre dudan pero siempre se decantan hacia el mismo lado y

hasta qué miseria se puede llegar para

de iniciativas al igual que toda la social democracia

lo que los que de verdad controlan en cotarro besterik gabe eskerrik asko otero jauna

eskerrik asko desde las antípodas pero reconocer la coherencia del señor damborenea yo creo que es justo creo que es la única persona de esta

con coherencia que ha defendido con vehemencia el acuerdo y que ha defendido con vehemencia el hurtar el debate también a este

una ponencia y por supuesto que seguimos cantando la internacional no se preocupe hasta que el mundo cambie de base claro que sí señores del partido socialista

el ceta el partido socialista

unidos o le preocupa una excesiva liberalización del libre comercio

compañeros y compañeras de ustedes en el parlamento europeo y sabía que iba a venir

con le pen pero el problema señores y señoras del partido socialista y lo vuelvo a decir que ya lo dije hace unos meses no es que nuestra delegación que bildu

con le pen el problema es que ustedes coinciden en esta votación con el partido popular con sus mismos argumentos ese es el problema y no otro ese es el problema y para el partido nacionalista vasco señor aguirre eztabaida babesten baduzu zergatik ez duzue babesten ponentzia sinple bat

eman behar du tratatu hauei buruz porque aunque fuera verdad que no se hayan traído iniciativas a este parlamento qué pasa que no podemos

es el problema que no podemos marcar los órdenes del día de lo que queremos que se pueda enmarcar en este pleno porque el parlamento de valonia también un parlamento

bélgica sí que puede participar sí que ha podido opinar y bloqueó el ceta durante un tiempo

aportó opiniones y aportó historias que luego podemos estar de acuerdo o no con ellas pero sí que pudo

porque no queremos hurtar ese debate a la ciudadanía vasca tampoco porque por mucho que se lleve mucho tiempo hablando

la ciudadanía vasca y no nos vamos a quedar con las ganas porque les anuncio que si esta ponencia sale rechazada

un parlamento digno de llamarse parlamento que represente a su pueblo para poder debatir sobre los asuntos que le afectan a su

hasta que se aburran y hasta que intentaremos también cambiarles de opinión probablemente lo tenemos complicado sobre todo con el señor damborenea pero no cejaremos en el empeño

muchas gracias señora presidenta ustedes estaban enredados con el ttip porque era estados unidos

la legislatura pasada si llega a ser con rusia no había problema pero como eran los yanquis pues había que y mientras tanto se han colado veinte tratados

la incoherencia es lo que les lleva hoy a la postura ridícula que están manteniendo todos ustedes aquí

hasta con los del brexit coinciden pero no sé por qué oiga si piensan así díganlo

qué les da vergüenza claro qué les da que no creen en la unión europea que no quieren la unión europea que no quieren el euro pues díganlo no pasa nada la señora le pen lo dice

y ustedes votan con ella pero no se molesten porque se les diga esto es que es así y como les dije también el otro día oiga al señor trump les felicitaron ustedes los demás no le felicitamos para nada

porque vamos a votar un no no no a ver que me entiendan nosotros votamos sí al tratado con canadá vale no votamos no votamos sí

votamos sí votamos en europa y lo votaremos en el congreso de los diputados claro ahora resulta que la transparencia es porque estaba en inglés entonces no era transparente

lo digo por comentar si hablamos de la transparencia así

se va a cargar el de méxico y el de canadá pues coincide con ustedes qué quiere que le diga hombre claro pero luego no nos vengan no es que a través de canadá los yanquis van a están en lo mismo

pero vamos claro el estado autárquico los monopolios

nadie puede vender no puede venir nadie

como los agricultores franceses ahora quemamos los camiones ahora quemamos tal están en eso

ese es su planteamiento ese es el que nos están trayendo hoy a esta cámara

el problema es que lo vota el pp pues qué mala suerte tienen ustedes yo qué quiere que le diga nosotros estamos a favor lo votamos en europa y lo vamos a votar y lo vamos a ratificar allí oiga es posible que algún estado europeo se lo

a lo mejor los griegos cogen y votan que no yo creo que sería malo para europa

pero ustedes estarían encantados porque lo que pretenden es que las cosas que pueden ser buenas no se hagan ese es su planteamiento en esta cámara y si van a pedir la comparecencia de los valones le ruego que la pida en la comisión de peticiones ruegos y demás cosas que hay por ahí

de bildu y de podemos ni se hagan trampas ni nos hagan trampas porque no hace falta una ponencia para conocer el posicionamiento de los grupos parlamentarios sobre el acuerdo de libre comercio con canadá lo conocen ustedes desde hoy mismo o necesitaban alguna ratificación más y para los socialistas no es lo mismo

ya negociado y acordado como el ttip que está en fase de negociación o de congelación no es lo mismo porque la fase en la que se encuentran los acuerdos no son las mismas

es distinto y no hay un acuerdo marco de libre comercio que valga para todos los países que quieran acordar con la unión europea pero sí hay un protocolo marco de oposición

sea cual sea el país con el que se pretenda negociar y acordar y los socialistas concebimos la política comercial de la unión europea como un instrumento de doble objetivo

justo al tiempo que protege y extiende los estándares europeos sociales

defendiéndolos del dumping de terceros países y en segundo lugar un objetivo el de promover los derechos humanos y estimular el crecimiento sostenible y la creación de empleos de calidad potenciando el desarrollo de nuestra industria y nuestros servicios y siendo esto así los socialistas

en la quiebra de los estándares europeos de protección medioambiental social y laboral lo digo para que quede claro y así consta en acta y luego no se malinterpreten algunas de las intervenciones que hacemos

le decía señor otero usted nos decía no hagan demagogia barata oiga que no hacemos demagogia barata cuando décimos que bildu felicitó por su elección a trump

recordando las importantes relaciones comerciales existentes entre los dos países es que salió públicamente no es que yo estuviera ahí es que salió así mencionado públicamente

en segundo lugar los socialistas vascos tenemos libertad de pensamiento y libertad de acción respecto a la acción sindical

y comisiones obreras otros no pueden decir lo mismo señor otero con respecto a otros sindicatos y se lo digo a usted por qué idoia mendia comentó en su momento el uno de mayo en las manifestaciones y otros compañeros y compañeras que asistimos a las mismas junto con los compañeros y compañeras de ugt y ccoo decía que estábamos de acuerdo con ellos porque el eslogan del uno de mayo

y otros no hacen ni caso a ese tema reclamaban

salarios justos pensiones dignas y más protección social y ante eso señor otero

los socialistas vascos estamos plenamente de acuerdo por eso estuvimos muy cómodos en aquella manifestación y manifestaciones del uno de mayo y por último a los socialistas vascos

y que pertenecemos al primer partido que decidió aliarse con compañeros y compañeras del resto del mundo para defender los derechos de todos y todas lo que de verdad nos asusta lo que nos da miedo no es lo que ustedes han estado comentando en esta tribuna

es que se levanten muros o se pretendan levantar muros para impedir que entre algo extraño

a lo que no conocemos por creer que de los otros lo del ellos lo del exterior siempre viene de ahí todos los males que nos acechan

es la tesis que comparten ustedes con otros ejemplos que tenemos ahora tan cerca

a abrir puertas para que otros entren para que entren otros mercados y para que nosotros y nuestros productos podamos salir fuera sobre la base de unas reglas unas reglas comerciales claras y sobre todo con unos derechos que nos ha costado mucho conquistar esos derechos estén garantizados para todos nada más y muchas gracias

en la comisión europea sea una patética mentirosa y antieuropea obsesiva

a los medios de comunicación lo que está colgado en la web de la comisión desde el año dos mil catorce sea

supongamos adicionalmente que todos los funcionarios y funcionarias que han participado con ella durante cinco años en las negociaciones del tratado

se hayan dejado vender o comprar por un plato de lentejas a las multinacionales y trasnacionales además de ser unos traidores a la causa europea vamos a suponer adicionalmente que todos los funcionarios y funcionarias veintiocho estados miembros que han revisado paso a paso

pues también sean incompetentes corruptos y que se hayan dejado comprar por las multinacionales pues yo no me lo creo

no me lo creo porque si no no hubieran aprobado por unanimidad bélgica incluida gobierno de tsipras incluido el acuerdo del ceta el tratado del ceta el treinta de octubre de dos mil dieciséis yo

todo lo que ustedes dos han afirmado aquí a lo largo de su intervención y adicionalmente me quedo también con la

alarmismo que nosotros no compartimos podemosek

galderak batzordeari desde el año dos mil catorce

quiere saber cuántas preguntas de podemos ha habido sobre el ceta

treinta y nueve preguntas a la comisión europea ninguna sobre el ceta

gonzález peñas noventa y ocho preguntas ninguna

lola sánchez caldentey ciento diez preguntas ninguna

estefanía torres martínez ciento quince preguntas ninguna

miguel urbán crespo setenta y cinco preguntas ninguna

y cómo no pablo iglesias turrión record absoluto trescientos cincuenta y seis preguntas ninguna

entonces desde que podemos entró en el parlamento europeo en dos mil catorce se han cursado setecientos noventa y tres preguntas a la comisión y ninguna

y eso demuestra el interés real que tenéis sobre el tema que es cero patatero no tenéis ningún interés sobre este tema de paso

entonces yo creo que el buen funcionamiento de la democracia exige que haya dudas que haya preguntas que haya debates interpelaciones debates contradictorios pero también yo creo que implica un mínimo de rigor intelectual no postureo y lo vuestro ha sido postureo

yo creo que además los tratados estos sirven también para algunas multinacionales

que son en muchos casos cooperativas irizar ederlan

y que nos va a permitir que desde euskadi también tengamos acceso